que se encuentran después de mucho tiempo y uno le dice al otro hombre manolo cuánto tiempo sin verte pues si la verdad bueno qué tal te va pues ahí vamos tirando y tú va tirando también

pues mira tengo una pequeña empresa y hacemos molinillos de café aiba molinillos de café y eso da dinero dice bueno no me quejo

pero como hacemos un montón yo siempre que escucho este chiste que es bastante malo hay que reconocerlo

me acuerdo del tren de alta velocidad y ahora me voy a explicar baina horren aurretik

y yo creo que a estas alturas lo que toca empieza a ser otra cosa toca hablar un poco claro

de la política de infraestructuras españolas y sobre todo de la alta velocidad española

más daño ambiental social y económico se va a hacer y es difícil explicar aquí en diez quince minutos la cantidad de razones por las que hay que parar la locura de la alta velocidad no creo que haya otro ejemplo en el mundo de insistencia de cabezonería en el despilfarro

y en las consecuencias económicas negativas que está teniendo y va a tener en el futuro

de alta velocidad el escenario empieza a ser tan grotesco que apelo desde aquí a la responsabilidad de ustedes y cuando digo ustedes me refiero a los partidos políticos al gobierno y también a los medios de comunicación a todos

descalabro y yo les invito a que repasen un poco las opiniones cualificadas a que revisen las cuentas a que dejen de hablar de los minutos que

a dejar de hacer propaganda barata a dejar de hacer política electoral con este tema porque los números a estas alturas son

a estas alturas ya es por el sentido común es por la protección del medio pero sobre todo como le dijo clinton a bush padre es por la economía

no tengo mucho tiempo de ahondar pero voy a poner unos datos encima de la mesa creo que no se van a poder cuestionar son todos de fuentes oficiales y empiezo

es el campeón del mundo en vías en kilómetros de alta velocidad por habitante multiplicando por cinco

a los que tiene alemania multiplicando por seis los que tiene china de la que tanto se habla de alta velocidad duplicando a francia que es la segunda

pero además es campeón en autovías y autopistas también por habitante y es

en utilización de la alta velocidad si miramos la utilización de kilómetros de ave y viajeros año vemos que españa está aquí aquí de pequeñito muy lejos de otros países incluso de países como francia que ya tiene una red de ave de más de dos mil kilómetros españa tiene una red de más de tres mil kilómetros tres mil doscientos y pico y la esperanza es ir

pero es que todo esto se ha hecho dentro de una política de infraestructuras de despilfarro en la que

parecía que no había fondo

cuando el secretario de estado de transportes de estados unidos fue a visitar algunas infraestructuras en españa era pepiño blanco el ministro de fomento en ese momento pepe josé blanco

el señor le dijo y yo creo que con muchísima ironía

ustedes son muy ricos nosotros no nos lo podemos permitir españa se lo podía permitir

pareciera que sí y cuando comparamos españa con alemania si miramos la inversión en infraestructura ferroviaria desde los años dos mil tres hasta dos mil quince vemos que españa ha invertido setenta y cinco mil millónes de euros de los que

en alta velocidad un ochenta por ciento mientras que alemania en esos mismos años ha invertido

con un producto interior bruto que triplica al español realmente había dinero y es algo curioso que se sigue prometiendo el ave a todo el mundo

brevemente a todos lados y el partido popular en vitoria está hasta buzoneando las maravillas

a partir del memorándum y a partir de los recortes que tienen entre otras cosas mucho que ver con la política de infraestructura con el agujero que se creó en aena por los aeropuertos

bueno pues en adif las cosas todavía son peor y los últimos tres años vemos que efectivamente la inversión en alta velocidad está siendo prácticamente

de lo prometido pues no sé en qué se va a quedar y es curioso porque no es que no hiciera falta meter dinero en infraestructura ferroviaria porque resulta

que hay en españa al año el noventa y dos por ciento son en cercanías y media distancia convencional para un ocho por ciento de alta velocidad

se le suma el avant y el alvia es decir se ha hecho todo ese gasto

en el despliegue para tener un ocho por ciento de viajeros en ferrocarril veinte millónes en ave estricto que llegan hasta treinta y algún millón si le sumamos los que van por tercer raíl y los servicios de media distancia

todo esto evidentemente no ha sido gratuito y detrás de todo esto

con un montón de deuda y la deuda está llegando a unos límites atroces y como decía antes en el chiste las líneas son deficitarias

mayor y está subiendo año a año el año dos mil dieciséis la deuda de adif alta velocidad para ese ocho por ciento de viajeros que mueve era de cerca de dieciséis mil millónes el dos mil diecisiete

esa cifra y todavía fomento está diciendo que va a elevar la deuda de gasto de la alta velocidad en otros dos mil y pico millónes de euros más para llegar a una deuda de dieciocho mil millónes de euros tuvieron que vender la mitad de aena

de euros esto va a quebrar esto lo sabemos todos y resulta que nos dedicamos todos a ir a levantar la mano y decir señor ministro señor ministro tráigame una línea más a mi tierra

una línea nueva de alta velocidad porque todo es prioritario es prioritario unir madrid con coruña es prioritario unir

con barcelona y es prioritario tener el ave en soria

en teruel etcétera se me está agotando el tiempo pero bueno de las reflexiones que quería hacer yo quería hacer una que me parece que es importante

a estas alturas los expertos ya han hablado ha hablado

dijo que no es necesario desde el punto de vista de interés público la existencia de servicios de alta velocidad

el que existan servicios de cercanías entre las ciudades que es lo que les están demandando

de la llanada alavesa por ejemplo a los que le van a intentar colar un tren de alta velocidad que no les va a dar más que problemas o en el dos mil quince

cuando dijo que el ave no tiene ni pies ni cabeza con veinticuatro millónes de desplazamientos al año nuestra red de ave no se puede veinticuatro millónes en el dos mil quince veinticuatro millónes de viajeros es lo que tiene solamente la línea parís lyon y el tribunal de cuentas francés

la red de la alta velocidad francesa esto lo que va a hacer unido a que en portugal han decidido parar es que esa línea estratégica

no vaya a ser de alta velocidad y lo que está provocando es que toda esa inversión en alta velocidad ha ido

del transporte de mercancías españa es el país de europa en el puesto veinticuatro en transportes de mercancías con un cuatro coma seis por ciento y está bajando cada año solo por delante de grecia chipre malta e irlanda y las necesidades están

o están en las mercancías hemos quedado una última fedea estudios de economía aplicada ha hecho ya el análisis sobre datos reales fedea sí fedea ginés de rús y todos los demás y todos los datos que ha dado hasta ahora son datos oficiales

es que evidentemente no hay rentabilidad ni aunque se le aplique el descuento social pero es que en cualquier lugar del mundo se sabe que el tren de alta velocidad

metrópolis que van a tener un uso muy grande las metrópolis las metrópolis estatales evidentemente son madrid con cerca de seis millónes y barcelona con algo más de cinco

la rentabilidad no va a conseguir darle la vuelta a más del cincuenta por ciento de la inversión resulta que las

suman entre todas un millón ochocientos y pico mil habitantes la tercera parte de cualquiera de esas dos aglomeraciones a día de hoy

el uso de barcelona y madrid el ave dividido entre tres contando con una buena previsión en dos millónes cortos y todavía se está intentando vender que el tren de alta velocidad va a llevar entre cuatro y cinco millónes

y aún y todo con estas tasas con estas tasas con las tasas de uso o la demanda de uso se está haciendo

que la línea de alta velocidad no va a tener una rentabilidad ni para pagar los costes variables de explotación y mantenimiento eso

madrid hendaya echen ahora cuentas del eje cantábrico mediterráneo a ver en qué se queda la cosa ustedes van a sacrificar y veo que no se quieren echar atrás en parar esto ustedes van a sacrificar están pidiendo

el cuerpo y van a tener que poner el cuerpo para nada eskerrik asko

las dos líneas de alta velocidad que el gobierno de españa ha presentado recientemente para construir

no son necesarias no las necesitamos

necesitamos en primer lugar porque ya existen líneas convencionales

obviamente en las que se puede renovar el trazado eliminando curvas

y por supuesto adaptándolas al ancho internacional a través del tercer hilo no solamente no las necesitamos porque ya tenemos líneas sino porque

ninguna línea de la alta velocidad española es a día de hoy rentable todas y cada una de ellas son deficitarias todas y cada una de ellas por lo tanto en el caso de la alta velocidad no podemos hablar en ningún caso de que estamos haciendo inversiones

haciendo gasto y esto tiene que quedar claro no solamente no van a ser rentables sino que ese gasto va a ser astronómico la línea pamplona vitoria se plantean por novecientos millónes dos mil si van por ezkio itsaso la de burgos gasteiz dos mil cuatrocientos millónes cuatro mil quinientos millónes entre ambas

de que la de burgos gasteiz ni siquiera va a servir para el tráfico de mercancías que es lo que necesita euskadi

el astronómico agujero financiero que el ave está creando en españa

desde mil novecientos noventa y dos se han dedicado desde ese año a vaciar las arcas públicas y allanarlas de telarañas y a cambio nos han

que posiblemente a nosotros nos hace mucha gracia pero a la unión europea no le hace ninguna

que con los fondos de cohesión no se juega y que cuando se utilizan los fondos de cohesión para

y ya en dos mil quince la comisión europea ha dejado claro que la política inversora de españa en el ave es absolutamente deficitaria y ha escrito textualmente hay riesgo de que las nuevas líneas no generen suficientes ingresos no es que haya riesgo es una realidad ninguna de ellas los genera

y si no son necesarias desde un punto de vista económico y financiero qué decir

nadie nadie está pidiendo líneas de alta velocidad en este país

nadie pide una línea de alta velocidad no son necesarias para la gente no son de interés general como se está diciendo el único interés que tiene es el de seguir haciendo negocio

y haciendo negocio con sobrecostes no justificados la primera línea de alta velocidad que se construyó en españa la madrid sevilla tuvo un sobrecoste del treinta por ciento la madrid barcelona del treinta y uno por ciento la y vasca

con un pequeño amago de chiste que hice en una comisión en una comparecencia de la señora tapia diciendo que a este paso a este paso cualquier día nos vamos a plantear hacer una línea de alta velocidad entre lutxana erandio y lutxana barakaldo y no creo que exagere mucho vistas las líneas que se han planteado en españa y la realidad es que

en marzo de dos mil diecisiete la comisaria europea de transportes violeta bulc dijo una cosa que no se puede decir más clara dijo

pero tiene que ser viable y tiene que ser viable porque si no se convierte en una auténtica

que nos está lastrando nos va a lastrar por décadas nada más muchas gracias

el primer punto de su moción dice lo siguiente el parlamento manifiesta que es prioritario impulsar un cambio de modalidad en el transporte de mercancías pasando gradualmente las mercancías de la carretera al ferrocarril efectivamente señor otero coincide plenamente el señor otero

primer punto con el gobierno el criterio del gobierno de españa

iñigo de la serna y también con el grupo popular el señor de la serna señor ministro presentó el catorce de diciembre de dos mil diecisiete

ante representantes del sector el plan de impulso del transporte de mercancías por ferrocarril dos mil diecisiete dos mil veintitrés

a la lectura de todo lo que informa el ministerio

que lo haya obviado como si no existiera pues sí señor otero existe el plan de impulso del transporte de mercancías por ferrocarril

y para su conocimiento señor otero en este plan se recoge y está escrito porque usted también dijo que nada de esto

se recoge que españa presenta medidas para garantizar la continuidad del transporte de mercancías por ferrocarril por todo el territorio español y por tanto también en euskadi por lo tanto señor otero usted

no dice la verdad en esta tribuna no lo dice porque lo ha leído

pero me alegra mucho que coincida con el señor ministro y con los planteamientos del grupo popular y con el gobierno de españa me alegra mucho porque mire también contamos con el plan de gestión dos mil diecisiete dos mil diecinueve elaborado por renfe mercancías

efectivamente el gobierno de españa está implantando medidas de apoyo a la operación a la operación ferroviaria en coherencia con la normativa comunitaria

europea también se apoya el desarrollo de autopistas ferroviarias para lo que ya se ha iniciado el proceso de implantación y como le decía

de renfe mercancías y esta necesidad de establecer políticas

varias actuaciones por mejorar la eficiencia del operador a esto se están dedicando medidas de este plan en sus diez meses de vigencia usted dice hoy en marzo del dos mil dieciocho no en su

lo que viene a decir es que hay que impulsar oiga algunos llevan impulsando esto tres años o cuatro y me extraña que usted no se haya enterado se ha enterado pero obvia pero usted tiene que adornar su intervención y lo obvia

se lo voy a repetir esta necesidad de establecer estas políticas pasa también por rediseñar su actividad comercial pasa por impulsar los tráficos internacionales pasa por identificar y gestionar los excedentes de material por la adecuación de plantilla a las nuevas necesidades y así en estos diez meses de vigencia de este plan de gestión de renfe de mercancías

pues está mejorando efectivamente se está mejorando la cuenta de resultados

con una variación de más el ochenta y ocho coma ocho por ciento lo que significa que se ha conseguido el equilibrio equilibrio básico y necesario para afrontar el reto de fomentar el transporte ferroviario de mercancías eso que le preocupa a usted hoy

hace bastante tiempo y para lo que han trabajado mucho para llegar a estos planes consensuados con el sector también

ha aumentado un nueve por ciento respecto al año dos mil dieciséis el volumen de mercancías transportado ha aumentado usted

mediante dotación de sistemas de gestión que permiten su planificación

y esos gráficos que usted nos ha enseñado son antiguos son

trampa nos hace trampa no son de este momento son antiguos y se debe iniciar un proceso de recapitalización con un plan de inversión en material adaptado a los nuevos escenarios de la infraestructura ferroviaria

en quiebra no sé si sabe pero hemos estado cinco años intentando superar y lo hemos conseguido la quiebra en la que estaba este país y hoy se puede invertir y se va a adquirir nuevas locomotoras ya que el material de tracción es determinante para la competitividad de la oferta

en diez puntos hay que tener en cuenta también la extensión del ancho internacional que deberá hacerse compatible para la explotación del ancho ibérico la expansión de la electrificación de la red en coherencia con el objetivo de descarbonización del sistema de transporte y con tensiones de tres mil

se va a invertir cien millónes de euros en la adquisición

se va a optar por el material más sostenible posible se van a poner en marcha ayudas para incentivar el uso del ferrocarril del transporte de mercancías

compatible con la legislación comunitaria y autorizada

en el transporte de mercancías veinticinco millónes de euros anuales durante cinco años para incentivar el uso

ferroviario para mercancías hay un empeño importante del ministerio para que españa llegue a la cuota modal del transporte de mercancías por ferrocarril como

estamos en el seis por ciento no en el cinco como dijo usted es que

el libro blanco del transporte que se redactó en dos mil once avanzaba la necesidad de descarbonizar el sistema del transporte y se establecía el objetivo de transferir

el treinta por ciento del transporte terrestre de mercancías y para el año dos mil cincuenta el objetivo es del cincuenta por ciento y en eso se está ocupando el ministerio y para eso tiene los planes de gestión primero y después

el transporte de mercancías y de acuerdo con la metodología aceptada por la unión europea

evita a la sociedad costes relacionados con la contaminación atmosférica la accidentalidad la congestión o el ruido valorados en veintiocho coma treinta y siete euros por cada mil toneladas km transportadas lo que en dos mil dieciséis un ahorro total de cuatrocientos veintiocho millónes de euros el ministerio ha iniciado el proceso de implantación de las autopistas ferroviarias en españa que se desarrollará en fases eso que usted también decía en la interpelación imposible inviable pues está en ello y se va a intentar y se va a conseguir luego nos propone paralizar proyectos

y mire señor otero nos ha explicado que no le gusta el tav pero es que esto ya lo sabíamos hace treinta años casi

y lo puedo entender que no les guste oiga pero es que otros opinamos que

son proyectos estratégicos que desde luego son necesarios y por lo tanto pues ustedes vuelven a lo de hace veinte años y le recuerdo que la alta velocidad en euskadi ya estuvo paralizada más bien estuvo secuestrada

para qué ha servido ha servido para algo no no ha servido para nada no han avanzado nada en esto no han avanzado no sé si avanzarán

antes estaban en contra de los puertos deportivos ahora están a favor antes renunciaban o rechazaban la política energética del gobierno la denunciaban y ahora llegarán a un acuerdo

también con ustedes cuente a todos sus afiliados y a todos sus simpatizantes que va a llegar a un pacto por la energía en euskadi cuéntelo

entonces creo que estamos en un momento que necesitamos proyectos estratégicos y este es un proyecto estratégico se han hecho las alegaciones y yo creo que están estudiando y analizando de manera profunda para poder llegar a aquellas

y en esa fase estamos por lo tanto yo creo que se va a poder avanzar en este sentido y poder conseguir que sea lo menos impactante posible

se tiene que impulsar un cambio de modalidad en el transporte de mercancías y que gradualmente podamos pasar de las mercancías por carretera al ferrocarril de hecho este gobierno no solo este sino el gobiernos anteriores han estado trabajando intensamente para que eso sea posible

impulsando una red mixta de alta velocidad que permita compatibilizar el servicio de viajeros de manera competitiva con el de mercancías

vías vías competitivas y que den el servicio adecuado a aquellas empresas que quieren utilizarla desarrollando

a los puertos en fin yo creo que múltiples ejemplos

pues sí pues nosotros tanto los dos grupos que sustentan al gobierno como el partido popular entendemos

con iruña pues bueno es una buena alternativa y nosotros además creemos que la propia conexión a través de

puede ser una de las mejores alternativas lo creo yo y lo digo no tengo ningún complejo por qué primero por funcionalidad segundo por economía temporal porque de alguna manera también eso puede ahorrar una serie de tiempos y puede hacer que ese servicio sea mucho más competitivo por trazado porque puede ser incluso más corto

múltiples beneficios y sin embargo pues como no podía ser de otra manera estamos en contra de la propuesta de eh bildu de unir la y vasca a través de otras vías

la línea actual incorporando el ancho estándar internacional por qué primero porque entendemos que podría causar un importante impacto en ámbitos urbanos segundo porque entendemos que no conseguiría la funcionalidad de la propia vasca dado que el trazado de alguna manera podría penalizar en cuanto a tiempos de viaje no lo haría competitivo ni para viajeros ni para mercancías incluso

impedirían compatibilizar por una sola vía las circulaciones de alta velocidad cercanías y mercancías sería muy dificultoso compatibilizarlo y por último se podría provocar

argumento a lo que decía el señor becerra muy probablemente el adecuar a esa situación probablemente pudiera ser incluso hasta más caro que el construir unas nuevas como se está haciendo no estamos de acuerdo con paralizar la conexión de alta velocidad entre vitoria gasteiz y burgos

de un corredor ferroviario que es estratégico para este país un corredor de alta velocidad del atlántico estrasburgo madrid lisboa que es

sino incluso también para la unión europea que está poniendo dinero para que ese proyecto se pueda desarrollar nosotros entendemos que el impulsar esa vía hace que las conexiones con

sean posibles porque en estos momentos esa conexión pues es relativa creemos que tiene bastantes más benéficos

entendemos que como viene siendo costumbre en ustedes quieran aplicar la política del no permanente

históricamente su estrategia ahora parece que también es la estrategia de elkarrekin podemos

está claro que la actual red ferroviaria requiere

necesita adaptarse a los nuevos tiempos necesita ser mucho más competitiva necesita ser mucho más sostenible mucho más eficiente y para eso hay que invertir aquí en muchos momentos de sus intervenciones hemos podido escuchar

de la construcción de estas infraestructuras lo deficitario incluso de la prestación de estos servicios de transporte yo les haría una pregunta díganme ustedes un solo transporte público que arroje beneficio uno en cualquier caso la inversión pública también está para eso que invirtamos públicamente no quiere decir que tengamos que obtener

no necesariamente por eso les pido por favor que me pongan un solo ejemplo de un transporte público

habrá muy poquitos no creo que les puedan alcanzar a decirme más de dos tres cuatro no lo sé

igual me sorprenden pero no creo en cualquier caso creemos que esta infraestructura estas inversiones son necesarias y que además

con el exterior con el resto de la meseta incluso con europa incluso

a terminar teniendo una red de alta velocidad lutxana barakaldo pues no sé si terminaremos teniendo eso pero mire

público eficiente eficaz y que verdaderamente fuera válido para los ciudadanos por qué no por qué no

y que de alguna manera entre todos vayamos desterrando el uso del vehículo privado hacia transportes que sean mucho más sostenibles

la utilización del vehículo particular o de transportes públicos que son evidentemente mucho menos sostenibles que un tren

mostrándose como ejemplo incluso de sostenibilidad y venir aquí con un glosario

de a tres impresos en color que me parece que de ecológico tiene bastante poco pero bueno en fin al fin y al cabo como ustedes siempre han sido

pediría un poquito de respeto por favor haber mesedez

hay cosas como la realidad que termina siendo tozuda si al final para que un país avance hacen falta inversiones de otro tipo y no

en su no permanente en su cerrazón en su bloqueo y en sus ganas de seguir que este país siga avanzando
en carro con bueyes y no en tren de alta velocidad gracias eskerrik asko andueza jauna

edo esan duzu que tenemos una deuda mayor aipatu duzu

ese va a ser el problema medioambiental que tenemos hablando de un tema como el tren de alta velocidad

el ayuntamiento de agurain manifiesta su oposición al tratado quinto del estudio informativo iruraiz

que los trámites oportunos acuerde la anulación total del proyecto de corredor ferroviario

unanimidad voto del pp a favor por cierto así que claro

que me diga que se están impulsando las mercancías y usted me habla de creo que treinta millónes me ha hablado treinta millónes de euros al año o una cosa así cuando se llevan gastando los últimos trece años una media de

seis mil millónes de euros en alta velocidad sin impulso de mercancías

el paso de las mercancías a ferrocarril por treinta millónes de euros al año fíjese fíjese todo lo que están empujando ustedes ahora me contesta fíjese tanto tanto están impulsando ustedes que el tribunal de cuentas europeo

un informe alertando de lo que estaba pasando que españa había recibido

europea y resulta que se había gastado el noventa y cinco por ciento del dinero en alta velocidad

al ferrocarril y usted me ha puesto los datos de un año un año pero en este informe es que españa junto a francia casualidad los dos países han desarrollado más la alta velocidad son los dos países que más porcentaje de mercancías han perdido en el transporte de ferrocarril y usted me habla de un último año de un último año en positivo esta es la media europea esto es alemania

es españa esto es españa un cuatro coma seis por ciento de las mercancías terrestres y un dos coma ocho por ciento de las mercancías totales eta zuek abiadura handiko

me da la sensación de que a estas alturas con todo lo que sabemos porque aquí se habla de que esto es estratégico es prioritario pero no se han discutido los datos y los datos son dramáticos entonces yo lo que digo es aquí hay tres motivos

uno es si uno es un ladrón ustedes me dirán nosotros no somos ladrones muy bien porque si uno es un ladrón algo puede coger ustedes me dirán nosotros no somos ladrones me parece muy bien la otra es ser un necio en el sentido

de alguien que no sabe ustedes me dicen que saben lo que está pasando pues solo queda una es que ustedes son fanáticos

ustedes no dan un paso atrás hace treinta años se podía discutir si esto podía ser interesante o no todo el mundo lo discutía

todo el mundo lo está rechazando por eso españa es el que más kilómetros de ave tiene por millón de habitantes porque todos los demás lo están rechazando y ustedes yo ya que esto va de ingeniería yo la última no les ofrezco una ingeniería muy sencillita

para que ustedes de una vez se bajen del burro eso es todo eskerrik asko

entiendo que parte del gobierno

y posiblemente son contrarios el problema es que claro entre bomberos no se pueden pisar la manguera y para garantizarse

pero podríamos haber llegado a un acuerdo perfectamente porque sí es viable utilizar las líneas de ferrocarril convencionales de hecho es deseable es una de las cosas que propone la comisión europea yo le diría

un medio de transporte eficiente el ferrocarril convencional el mismo que el tren de alta velocidad se está cargando

usted mire como está evolucionando el ferrocarril convencional en españa y verá cuales son las consecuencias ha hablado usted de facilitar la vida a la ciudadanía cómo facilita el ave el tren de alta velocidad la vida a la gente de la sakana

cómo les facilita la vida qué interés general se puede defender

y tampoco el transporte de mercancías habla usted de eficiencia de competitividad no hay ferrocarril o no hay medio de transporte menos competitivo que el tren de alta velocidad y más inviable tampoco y esto lo ha dicho la comisión europea y además la comisión europea

dice expresamente la comisión europea la política de inversiones del gobierno de españa se ha centrado más

que en su mantenimiento y ha favorecido una extensa red de transporte de viajeros en detrimento de las redes para mejorar el transporte de mercancías lo ha dicho en dos mil quince la comisión europea

efectivamente es que es tozuda la realidad la realidad es tan tozuda que la propia comisión europea ha abierto un expediente por ejemplo a renfe

la alta velocidad en competencia con otros medios de transporte que no están siendo tan subvencionados y eso va en contra de las directrices europeas pero ahora mismo

de hormigón inútil y despilfarro de dinero público como no ha habido en este país jamás los setenta mil millónes de euros de dinero gastado

equivalen a todo el dinero que ha desaparecido de la hucha de las pensiones desde que el partido popular llegó al gobierno son más de lo que se gasta en educación o en sanidad en todo un año y esto es una orgía un despilfarro que como ya se ha dicho

va a reventar y va a reventar posiblemente desde la comisión europea que ya le están diciendo al gobierno de españa que está haciendo

a adif lo está escondiendo no como déficit público porque quiero recordarle que el rescate financiero en dos mil doce fue de solo

el doble de lo que nos tuvo que dar europa en el rescate financiero haga las cuentas

señor becerra le repito no me haga trampa el plan de ayudas

está completamente contrastado con la comunidad europea

comunitaria ha hecho un informe sobre el plan de ayudas no me retuerza la información no sean tramposos

encima de la mesa que sean con sentido común y lógicos no retorcer determinados datos y argumentos señor becerra lo más deficitario hoy es

que la estructura territorial de españa no tiene nada que ver con la de alemania nada que ver nada que ver a usted le interesa comparar algunas cosas pero no son comparables

que aquí tenemos muchos más kilómetros tenemos mucho territorio sin poblar pero hay que comunicar o es que ustedes están en contra de que podamos unir

con euskadi con parís están en contra de eso a qué aspiran ustedes a qué aspiran ustedes cuál es su proyecto de futuro a qué aspiran pues en eso estamos en eso estamos señor otero

sorprende por otra parte el tiempo que se ha tomado navarra para decir que rechaza este trazado de vitoria ni durante los meses de dibujar el anteproyecto este ha dicho nada

lo ha dicho a mitad de marzo qué casualidad qué casualidad ya veremos ya veremos de donde viene esto no se preocupen

por vitoria al mediterráneo pasando por pamplona un proyecto

como le decía para álava y para vitoria y que queremos que se haga con el menor impacto posible y para ello habrá que analizar profundamente las alegaciones y trabajar conjuntamente entre administraciones y también con los sectores afectados

esto no es un me gusta o no me gusta vaya simpleza para un proyecto de estas características vaya simpleza usted ha dicho me gusta más ezkio oiga fíjese es que me gusta

pero vamos a ver ustedes están apostando por dejar aislada

ustedes son los que apoyan al gobierno dos partidos que apoyan al gobierno y el gobierno qué pasa que lidera esa estrategia de dejar aislada a vitoria y a álava pues apuntan maneras oiga apuntan maneras ya dejará usted aquí argumentos donde efectivamente están trabajando ustedes porque

un proyecto estratégico y forme parte de esa y vasca como un núcleo de conexión importante no a tierra de nadie gastando el doble de lo previsto y con un impacto mucho mayor por lo tanto ese me gusta nos lo puede explicar por favor me preocupa mucho que les parezca mal que alguien

tenga interés en conectar las ciudades españolas los territorios de españa de conectarnos con europa

que no les preocupe que alguien que gobierna en euskadi pretenda renunciar a proyectos estratégicos para una de nuestras capitales recuerdo la capital de euskadi territorio vitoria y álava por lo tanto señorías es preocupante qué vamos a hacer nosotros ante la enmienda de transacción

nosotros la primera el primer punto superamos con creces la actividad del gobierno va muy por delante de lo que se dice aquí por lo tanto el gobierno ya lleva tres años impulsando la conexión y el cambio de modalidad en el transporte de mercancías por ferrocarril pide paralizar los proyectos cosa que ha quedado claro entiendo que no vamos a apoyarla y en el tercero el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que trabaje con el gobierno español para reformar las vías actuales adaptando su trazado y ajustándolo al ancho internacional para posibilitar que den respuesta a las nuevas demandas

usted no se ha leído la respuesta que le dio la consejera creo que no se la ha leído

le dijo la señora consejera tanto el gobierno vasco como el ministerio de fomento

qué características va a tener no me voy a referir a la y vasca como usted bien sabe aunque diga que no es cierto la y vasca sí tiene esas características de tráfico

a iruña y hacia el mediterráneo porque así se ha definido por ambos gobiernos por el gobierno vasco y por el gobierno de navarra y el gobierno de españa por lo tanto este punto sobra ya se está haciendo me preocupa que los grupos del gobierno apoyen este punto porque entonces ponen en duda la palabra de la señora consejera
me preocupa nada más muchas gracias eskerrik asko

en la variedad está el gusto pero desde luego si hubiera estado atenta a mi intervención se hubiera dado cuenta que he dado tres razones de peso para apoyar eso en cualquier caso

me gusta en cualquier caso decía machado que los hay que confunden valor y precio y qué cierto es y con el paso del tiempo sigue pasando eso porque miren yo le he hecho una pregunta a los dos grupos firmantes de la transaccional yo les he preguntado les he dicho que me dijeran

lo tenían muy fácil podían haber dicho beneficio económico ninguno pero todos tienen un beneficio beneficio social

han sido incapaces de ver la rentabilidad social de tan solo un solo transporte público no de este tan solo un solo transporte público qué le vamos a hacer en cualquier caso señor otero mire toda esta banda

y de fanáticos pues tienen mayoría parlamentaria qué le vamos a hacer lo que es una lástima es que esta sociedad no sepa reconocer en justa medida lo honrados lo honestos lo inteligentes y lo poco fanáticos que son ustedes porque para ser tan buenos en qué pocos sitios gobierna señor otero mira usted tiene
mucha costumbre isiltasuna mesedez mire usted ha mirado a alemania

a ver si ve también en alemania otros ejemplos que le puedan servir para aquí

el señor becerra que mira que si hay un transporte que tiene beneficios es el ferrocarril convencional y en ese caso le tengo que dar la razón tiene dos beneficios principales en el ferrocarril convencional

que cuando llega a destino parece que se conocen de toda la vida incluso hay veces que en ferrocarriles convencionales puede llegar usted hasta envejecer

a mí me guste mucho más el tren de alta velocidad decía usted que la comisión europea que se opone que tal pues no sé si se opone pero desde luego lo financia así que si lo financia mucho mucho tampoco

se opondrá por tanto en fin ya vemos que

varios modelos y que a ustedes no le gusta el modelo de gestionar de españa en fin si usted me pone en una balanza el modelo de gestión del estado pues igual yo en muchas cosas sobre todo con el gobierno actual

ese modelo en la balanza en el cual hay que pagar cuarenta y cinco millónes a una empresa por no hacer nada o incluso hay que volver a hacer una inversión tan importante como la anterior para poder hacer efectiva una planta de